eta estatukoaren arteko diferentzia eta hori ere aipatu genuen momentu horretan por qué los veinte las explotaciones de veinte cabezas

entendemos precisamente lo que tratamos de buscar es la estructuración del sector y por tanto

entendemos que la mayoría de explotaciones no participan en programas de calidad los ingresos procedentes de la actividad agraria de esas explotaciones supone un porcentaje

supone un porcentaje mínimo de la actividad que tienen y que el peso que tiene el sector de vacuno de leche en esas explotaciones sobre el conjunto de ingresos agrarios es muy bajo

por decirle unos números representa el treinta por ciento del total de explotaciones y es lo que me va a decir lo sé

y el cuatro coma cuatro por ciento del total de la cuota de campaña dos mil catorce dos mil quince

sobre las explotaciones que estructuran el sector y que suponen la parte más importante y la que más sufre como consecuencia de la entrada en vigor de esta normativa láctea

bai sí desde el escaño doy por reproducida la pregunta

eskerrik asko sailburu señorías ustedes nos indican en la respuesta dada a mi grupo el diecisiete de noviembre

en una situación precaria a consecuencia de la crisis económica y del incremento del paro que no habiendo necesitado recurrir a las ayudas sociales lo están haciendo asimismo reconocen ustedes las circunstancias actuales que han despertado una nueva realidad que el patrimonio no se pueda liquidar a tiempo para atender las emergencias

para cumplir el mandato del parlamento en los términos expresados y apelan a la necesidad de hacer una reflexión previa sobre las consecuencias de cualquier cambio puntual de la normativa

se remite al artículo veinticuatro punto uno del decreto de la renta de garantía en la cuestión que nos ocupa señor consejero que establece que cualquier miembro de la unidad de convivencia que posea un bien inmueble en posesión o usufructo diferente de la vivienda habitual

no podrán acceder a las prestaciones sociales se deniega el acceso a las ayudas tanto a las personas que poseen un pequeño terreno como a las que poseen una segunda vivienda sin tener en cuenta que no puedan beneficiarse de ellos

bien por sus características en mal estado de conservación o porque no logran venderlo por las circunstancias actuales del mercado inmobiliario consecuencia de la crisis económica

todas las especificaciones relativas a ingresos y patrimonio de las que carece

a las entidades gestoras utilizar discrecionalmente el ocho por ciento de la asignación que les corresponde en base a que algunos ayuntamientos han incrementado con cargo a sus propios recursos una línea específica de ayudas habilitada precisamente para estas situaciones excepcionales

en la orden de las ayudas de emergencia social y en el propio decreto y sin embargo muchos otros ayuntamientos que carecen de recursos propios

que es necesario modificar el decreto cuatro barra dos mil once a fin de que puedan acceder a las ayudas de emergencia social las personas

sin depender de que su ayuntamiento cuente o no con presupuesto propio y sin perjuicio se puedan establecer todos los controles que sean necesarios para ellos y entendemos que corresponde al gobierno hacer las modificaciones oportunas y que lo debe hacer de manera urgente porque quien tiene la necesidad así lo está pidiendo señor consejero acabamos de conocer el sociómetro vasco de noviembre sobre las desigualdades sociales y prestaciones la mitad de las personas encuestadas percibe que el veinticinco por ciento de la población vasca está en situación de pobreza en euskadi

y que las consecuencias de la pobreza son no poder vivir en una vivienda digna sufrir pobreza energética o no poder comer carne y pescado dos veces por semana asimismo el veintitrés por ciento de las personas encuestadas percibe que ha empeorado la atención a las personas en situación de pobreza

señor consejero el cincuenta y uno por ciento percibe que las ayudas no llegan a las personas que lo necesitan
y el cincuenta y siete por ciento opina que deberían llegar a más personas eskerrik asko

a esta pregunta oral como usted ya ha señalado la mayor dificultad que se nos presenta es que estamos limitados por el valor del patrimonio máximo admisible establecido en la propia ley

dado que en el mandato del parlamento la proposición no de ley veintitrés barra dos mil quince plantea únicamente modificar el decreto de las aes era imprescindible buscar

respetando la jerarquía normativa y sin cuestionar la citada ley ni el conjunto del sistema de garantía de ingresos gure sailean lanean jarraitu dugu

y la inclusión social establece entre los requisitos que deben cumplir las personas beneficiarias de las ayudas de emergencia social el siguiente no disponer de un patrimonio cuyo valor sea superior a cuatro veces la cuantía anual de la renta básica

en el supuesto de ausencia total de recursos en función del número total de personas relacionadas entre sí por los mencionados vínculos el valor de patrimonio se determinará de conformidad con lo regulado en el capítulo segundo del presente título

la posibilidad de exceptuar el cumplimiento de tal requisito mediante disposición reglamentaria por lo tanto permítame señora sarasua que

concluya diciendo que se trata de un requisito establecido por una norma con rango de ley cuya modificación exige una

legal del que el gobierno no es competente sino este parlamento es decir no cabe exceptuar el requisito establecido
mediante un decreto que sí sería competencia del gobierno pero no el de la ley eskerrik asko toña jauna gai zerrendako

usted lo sabe bien pudo haber sido tan solo una opción hace diez años pero hoy es una necesidad el inglés

se ha convertido en la lengua del mundo globalizado en la referencia fundamental en la investigación científica y tecnológica y en la herramienta básica

su conocimiento es por tanto y de manera interconectada un elemento de igualdad social y de modernidad de un país que como el nuestro euskadi debe

en el panorama europeo e internacional es en este mundo globalizado en el que sin inglés no es se esté in sino que se está directamente

de la ciencia out de la innovación y de la internacionalización

con fecha siete de mayo de dos mil catorce usted señora compareció ante la comisión de educación de esta cámara

fueron espectaculares el avance en el conocimiento del inglés era extraordinario mientras que el euskera el castellano y las materias impartidas en inglés

establecidos para la evaluación se ganaba muchísimo sin perder nada al contrario de lo que algunos agoreros habían pronosticado en concreto en tercer curso de la educación secundaria el veintisiete por ciento del alumnado los grupos met uno consiguen un nivel be dos en inglés y el cuarenta y uno por ciento un nivel be uno es decir un sesenta y ocho por ciento

marco educación trilingüe tiene un nivel be uno o superior en contraste con ello entre el alumnado de los grupos de control solo el tres por ciento alcanza el be dos

o lo que es lo mismo únicamente un diecinueve por ciento tiene un nivel be uno superior el porcentaje de alumnos que alcanzan o superar el nivel de inglés entre los grupos

repito catorce años el sesenta y ocho por ciento del alumnado es decir casi el setenta por ciento del alumnado alcanza un nivel be uno o be dos del marco de referencia europea de las lenguas frente

casi veinte por ciento que no estando en el marco de educación trilingüe no lo logra la diferencia es muy significativa y se produce

mientras unos los que no hacen marco de educación trilingüe avanzan cuarenta y seis coma dos puntos en ese periodo

marco de educación trilingüe avanzan noventa y siete puntos y eso no lo digo yo lo dice la evaluación científica y usted la conoce bien porque esto es lo que señala el propio informe

con las horas de exposición a esta lengua algo que ocurre de forma similar en el caso del euskera hasta un límite de utilización como usted bien sabe lo que indica

pasa de ser una asignatura a ser el instrumento para el aprendizaje de otras materias es decir

esa es precisamente la filosofía del marco de educación trilingüe convertir a las tres lenguas que conviven en nuestro sistema educativo en objeto e instrumento de aprendizaje hete aquí que transcurridos dieciocho meses de aquella comparecencia este parlamento y la comunidad escolar seguimos desconociendo la evaluación

del marco de educación trilingüe dos el grupo más numeroso y no conocemos ni la evaluación ni las conclusiones finales de este proceso

es una situación que consideramos bastante inexplicable

que el marco de educación trilingüe fue ideado por esta administración educativa vasca por este gobierno vasco por este

no como una experiencia más en el tratamiento de las lenguas en la educación vasca

y científica tomar las decisiones oportunas que nos permitieron avanzar en el euskera consolidar el bilingüismo y mejorar sustancialmente el conocimiento del inglés tal y como demanda la sociedad del siglo veintiuno

más que retroceder pues si bien nuestra comunidad autónoma está a la cabeza

esta buena posición de ningún modo tiene su reflejo correspondiente en lo referente a la introducción de la enseñanza en inglés que a duras penas llega a la media española en la educación primaria y queda por debajo de la misma en la educación secundaria obligatoria

si nos referimos al alumnado de la red pública que estudia al menos una materia en inglés

en la red pública en la mitad del sistema de diecisiete comunidades autónomas

porque si durante los tres años del marco de educación trilingüe se procuró que el inglés llegara a todo tipo de alumnado guardando el equilibrio entre ambas redes educativas hubo

la situación señora en estos tres años se ha desbocado según datos de su propio departamento el curso dos mil catorce dos mil quince el número de centros concertados

doscientos cinco centros de la red concertada ikastolas incluidas

a ciento diez en la red pública y en lo referente al alumnado el dato todavía es más preocupante cincuenta y ocho mil seiscientos cuarenta alumnos en la red concertada

yo creo que esto señora le tiene que mover a usted a una reflexión y a una rectificación no se trata de que los alumnos de la red concertada reduzcan sus posiciones rebajen sus posiciones sino que la red pública mejore las posiciones en las que está

un buen conocimiento del inglés tiene que ser patrimonio de todo el alumnado vasco no es suficiente que llegue a determinados centros precisamente a aquellos que

es muy bueno para la educación vasca que la educación concertada llegue a ser trilingüe en poco tiempo es un mérito y un esfuerzo que valoramos muy positivamente

con su red qué pasa con la red de la que es usted titular qué pasa con la educación pública cómo podemos decir que apostamos por la equidad educativa si en vez de inglés para todos por la vía de la generalización progresiva con un plan ofrecemos solo para algunos las consecuencias personales laborales y sociales no pueden ser otras sino la desigualdad

he de comenzar diciendo que comparto varios aspectos con usted efectivamente es de reconocer que el marco de educación trilingüe ha supuesto un paso hacia la

considero que es importante recordar y reconocer las bondades del programa cuyo objetivo teórico compartimos en gran parte sin embargo señora celaá es honroso también saber reconocer que siempre existe margen de mejora

de que también existe margen de mejora en el marco de proyectos trilingües y plurilingües que estamos desarrollando en estos momentos precisamente es ahí donde radica el poder de la evaluación en su enorme utilidad en un proceso de mejora continua y es esto lo que estamos haciendo analizar evaluar y tratar de mejorar el sistema hasta alcanzar el marco idóneo que nos permita la generalización de la educación trilingüe y plurilingüe en nuestro sistema educativo

la experiencia previa del proceso de experimentación del marco de educación trilingüe tanto en la primera fase met uno como en la segunda met dos zeuk adierazi duzun legez

ponía de manifiesto que la utilización de un tercer idioma como lengua vehicular de aprendizaje de otras materias mejora sustancialmente la competencia lingüística en dicho idioma

asimismo nos mostraba la evolución experimentada en la competencia lingüística en euskera

repito la correlación era clara y positiva en el caso de inglés y del euskera es decir cuantas más horas en euskera e inglés mayor competencia de dichas lenguas

del inglés está directamente relacionado con el grado de bilingüismo en euskera y castellano esto es a mayor grado de bilingüismo de conocimiento simultáneo de euskera y castellano de forma equilibrada más progresa el conocimiento del inglés cabe destacar además en esta fase es experimentación

según la cual un veinte por ciento del currículum debía impartirse en cada lengua estas fueron las conclusiones más destacadas de la evaluación

en lo que respecta al rendimiento en la tercera lengua en este caso el inglés

citar además que las pruebas de lengua inglesa fueron construidas como en la anterior ocasión

y respondían a los estándares internacionales del marco común europeo de referencia para las lenguas

hemos observado que existe correlación positiva entre el porcentaje de horas de impartición y los resultados de compresión lectora en euskera y en inglés mientras que en castellano es inexistente

del currículum en euskera esta circunstancia no se cumple en el caso del castellano

por supuesto toda la información extraída de dichas experimentaciones ha servido y sirve de base en el diseño desarrollo y ejecución de los actuales proyectos básicamente trilingües y plurilingües

dado que existen otros pilares básicos que sustentan y que no podemos obviar

no solo no van a perder fuerza sino que se están consolidando sobre la base del bilingüismo en el marco y con el horizonte de una educación plurilingüe es de la perspectiva ineludible de conseguir ciudadanos y ciudadanas plurilingües con un conocimiento suficiente de al menos una lengua extranjera como ya le contesté recientemente en una de las preguntas que me hizo por escrito

prestando apoyo y colaborando para que progresivamente un mayor número de centros educativos tanto de la red pública como de la concertada

que se concibe como una herramienta para el cual el alumnado logre las competencias lingüísticas definidas en el perfil de salida del alumnado
definido a su vez en el marco de educación de heziberri dos mil quince eskerrik asko

la respuesta lo que me parece de un contraste casi inasumible

teniendo usted toda esa información a su alcance al alcance del gobierno vasco usted no haga un proyecto de generalización y usted mantenga mantenga la escuela pública fuera de los sistemas internacionales

internacionales de modernización lingüística porque le recuerdo señora que la escuela pública es usted usted es la titular de la escuela pública y le recuerdo señora uriarte que mientras tenemos cuántos

y esto solo puede deberse a dos cuestiones una

otra a que no tienen convicción si no tienen recursos oiga la responsabilidad ya sabemos dónde reside y si no tienen convicción es que usted no tiene convicción

la convicción para introducirse precisamente en un sistema de modernización lingüística fruto de la revolución de las tecnologías de la información contemporáneas nada menos que la mitad del sistema educativo vasco que se está quedando atrás repito de diecisiete comunidades autónomas la undécima eso usted no lo puede tolerar

proyectos que habían empezado hacía años pero el que usted tiene evaluado científicamente el que verdaderamente usted tiene evaluado científicamente y subvencionado pagado financiado por la administración educativa vasca

y usted ahí tiene resoluciones científicas y puede decir todo es susceptible de mejora por cierto

de seguir extendiendo el marco de educación trilingüe por mucho que sea susceptible de mejora porque la mejora se hace andando caminando

es que usted tiene la obligación de liderar este proyecto

no la disponibilidad no la opción sino la obligación de liderar este proyecto y de hacer un proyecto de generalización progresiva de trilingüismo y aquí no valen escusas no valen escusas de falta de formación de los profesionales

de su mandato pero no vale esa escusa tampoco porque es que eso sería tanto como decir que los profesionales de la concertada están mejor formados que los profesionales de la pública

ni tampoco vale que la educación pública no quiera oiga la educación pública tiene que tener la convicción

el euskera y el inglés no son adversarios no suman cero usted misma lo ha dicho no se trata de que a más inglés menos euskera a ver si nos vamos a pasar y va a ser

no acepta por tanto usted tiene la obligación de hacer un gran movimiento de movilización con su red con la escuela pública para que la escuela pública a doblar las cifras que en este momento tiene y eso en un tiempo récord porque usted tiene todo el patrimonio científico con los resultados de la evaluación que como usted ha dicho está hecha por las instituciones más prestigiosas e internacionales nada menos que la universidad de cambridge y pisa

pero yo creo que es claro el objetivo en el que estamos trabajando para alcanzarlo

con el objetivo de que el alumnado alcance con carácter general una competencia comunicativa avanzada en euskera y castellano y suficiente en inglés al finalizar la educación obligatoria sin excluir la posibilidad de adquirir conocimientos básicos en una cuarta lengua en aquellos centros que así lo prevean en sus proyectos lingüísticos el carácter

que posee en relación con la otra lengua oficial castellano siendo objetivo del sistema educativo vasco

en sus usos sociales por ello promovemos la consolidación del bilingüismo en el marco de una educación plurilingüe

para ello el euskera está necesitando un tratamiento preferente que compense la desigualdad del uso social entre las dos lenguas oficiales

en euskera y castellano y suficiente en la primera lengua extranjera hori guztia lortzeko helburuarekin

eta hizkuntzen didaktikaren inguruko prestakuntzan así pues destinamos ayudas a los centros en desarrollar proyectos trilingües o plurilingües

en el curso dos mil catorce dos mil quince fueron doscientos cincuenta y cuatro los centros participantes de los cuales ochenta y dos pertenecen a la red pública y ciento setenta y dos a la red concertada en el curso dos mil quince dos mil dieciséis son trescientos quince los centros que están desarrollando proyectos plurilingües ciento diez centros públicos y doscientos cinco centros concertados

hace tan solo unos pocos años y todo no es solo cuestión de dinero

quisiera señalar además que nos encontramos ya cerca de alcanzar el objetivo que nos habíamos planteado de conseguir la mitad de los centros de primaria y secundaria

la experiencia adquirida mediante la fase experimental las evaluaciones realizadas los recursos destinados y el tratamiento integrado e integral de las lenguas permitirá alcanzar nuestro objetivo

para que el alumnado alcance una competencia avanzada en euskera y castellano y suficiente en un tercer idioma a finalizar la educación por tanto

que mejorar las evaluaciones realizadas y los resultados obtenidos nos indican que vamos por el buen camino aquí no se trata exclusivamente

se trata de coger todo lo bueno que hay de las distintas experimentaciones intentar

de la noche a la mañana creo que estamos en el buen camino el número de centros que se van incorporando a los proyectos plurilingües nos lo están avalando

el gobierno vasco en el exilio crónica de una esperanza dokumentalari buruz llanos andrea

gracias señora presidenta señora consejera el documental el gobierno vasco en el exilio crónica de una esperanza

ante representantes del actual ejecutivo vasco y representantes de diferentes partidos se trata de un largometraje y de una serie documental de siete capítulos en el que han participado prestigiosos profesores de la universidad del país vasco y de la universidad de deusto

para una entidad que parece que tiene problemas económicos pues a pesar de eso fue metida en un cajón por decisión parece del actual director eduardo barinaga también al parecer porque era incompatible con otros proyectos

también nos han llegado noticias de que el director de etb llegó a descalificar esta serie asegurando muy ufano

no se emitiría y que si se le obligaba a emitirlo lo programaría en el horario de teletienda parece ser también que una llamada desde lehendakaritza el pasado verano le obligó a cambiar de decisión pero

visiblemente molesto por la llamada decidió programar la serie en horario

parece existir una mala fe en torno a este proyecto tanto por el horario de programación como por el corte súbito de los títulos de crédito al final de cada emisión

y al respecto ha habido quejas emitidas a la dirección de e i te be

nosotros le queremos preguntar señora consejera nos puede dar las razones por las que se retrasó la emisión de este documental por qué después de presentarlo a bombo y platillo se emite en un horario tan poco profecticio es cierto

para que por fin se emitiese el mismo eskerrik asko

dando innumerables explicaciones en relación a la fecha de emisión del documental titulado el gobierno vasco en el exilio

sin embargo no lo voy a hacer porque la fecha de emisión se ha decidido por una simple razón de peso la celebración del aniversario de la constitución del primer gobierno vasco así se acordó en el momento de presentación de la serie entre el director de e i te be eduardo barinaga y el director de la serie ander landaburu con motivo del aniversario

como finalmente se ha hecho sino en octubre de dos mil dieciséis coincidiendo de este modo con el ochenta aniversario

a las peticiones de las personas que habían participado en su realización que reclamaban su pronta emisión aipatutako dokumentalaren

el retraso deliberado existe lo que no es entendible

por parte de la dirección de las dificultades presupuestarias que tiene el ente

en un documental que piensa tardar dos años en emitir dos años en emitir no tiene ningún sentido no tiene ningún sentido

que es una serie de calidad y que ayuda al conocimiento de la historia del país vasco y creemos que por ello

tratado mucho mejor desde el punto de vista del horario del que se ha tratado porque por ejemplo con otro documental de las mismas características parece que eso sí estudiado por la dirección

que es un documental producido por baleuko que no nos olvidemos era la productora en la que participaba el actual director de e i te be

a las diez y media y se ha hecho todo tipo de promociones y presentaciones por ejemplo folletos como este

que el que se hizo con el otro documental y ha habido quejas claro que ha habido quejas recientemente un grupo de destacadas personalidades de la universidad y la cultura del país vasco y navarra entre quienes destacan los rectores de la universidad del país vasco gregorio monreal y pello salaburu

a la dirección de e i te be solicitando un cambio de horario así como la emisión completa de los

a estas personas la directora de e i te be como la que dio el otro día en el consejo de e i te be

no tiene ningún sentido es la misma que usted ha dado hoy aquí que se iba a dar el año que viene

que se compre un programa de calidad para darlo dos años más tarde eskerrik asko llanos andrea

señora llanos como le he dicho en mi primera intervención la emisión del documental en el mes de octubre fue acordada entre la dirección de e i te be y el director de la serie

la dirección de e i te be propuso a la productora y al director de la serie un planteamiento más íntegro y global para el dos mil dieciséis con motivo del ochenta aniversario del primer gobierno vasco dicho planteamiento consiste en cuatro documentales dirigidos por jóvenes realizadores que traerán a día de hoy los valores que rodearon al lehendakari aguirre y su gobierno

además de una serie de eventos y exposiciones este era el motivo por el cual se consideraba

y complementaba a la perfección el proyecto en esta efeméride en dos mil dieciséis

documental se decidió adelantar un año su emisión a octubre de dos mil quince en cuanto a la hora de emisión es cierto que esta siempre resulta discutible no obstante la dirección de e i te be atiende siempre a diversos criterios a la hora de seleccionar y planificar su programación

el programa batallón de gernika que usted ha mencionado y ha tratado de comparar con el documental que hoy nos ocupa

realizada con una productora vasca una productora francesa euskaltel y etb tiene factura cinematográfica y aúna testimonios vivenciales de gudaris y familiares

efectos especiales físicos y digitales material de archivo inédito por todo ello por sus características específicas se ofreció como estreno en el espacio la noche de batallón de gernika esperanza de libertad como una apuesta adecuada para dicho espacio

el problema que surge ahora es que la uci pretende copiar para el dos mil dieciséis el sistema utilizado en el ciclismo masculino

en cualquier caso estamos en contacto tanto con los organizadores de la prueba como con e i te be para analizar las posibilidades existentes al respecto
y haremos lo posible porque esta pruebe esté el próximo año en el calendario de worldtour femenino eskerrik asko

en directo como mínimo de la última etapa de este modo la entidad organizadora está analizando la posibilidad de organizar una vuelta de cuatro o cinco etapas con retrasmisión en directo de la última etapa y grabación en diferido de treinta minutos de las anteriores etapas

sí gracias presidenta muy bien señora consejera hoy se está ganando el sueldo con todas sus intervenciones tiene una pregunta

el palacio bellas artes de san sebastián fue declarado bien cultural inventariado de euskadi por orden de cuatro de marzo de dos mil quince firmada por usted mismo por lo tanto hace

la sade propietaria del palacio ha derribado recientemente su cúpula el gobierno vasco es el máximo responsable de la conservación del patrimonio cultural vasco siendo esto así le pregunto qué decisiones va a tomar el gobierno en relación a este asunto

va a ejercer sus competencias cuándo y cómo eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko uriarte andrea zurea da hitza

me temo que han sido numerosas las ocasiones en que este gobierno se ha pronunciado al respecto del tema de bellas artes

la última ha sido remitida este mismo miércoles como mediante respuesta oral en este estrado por ejemplo el pasado treinta de octubre

puedo deducir de su pregunta aún tiene usted dudas sobre la responsabilidad de la conservación del bellas artes pues bien la conservación de un edificio esté o no protegido

por supuesto también en el caso del palacio bellas artes de san sebastián eta erakunde publikook

sí gracias presidenta yo no le preguntaba tanto por las cosas que han venido ocurriendo en los últimos tiempos sino en concreto si el gobierno vasco va a asumir

vasco y qué medidas va a tomar en las próximas semanas o en los próximos meses para resolver esta situación en todo caso efectivamente podemos repasar algunos hechos y observar si el gobierno vasco ha cumplido o no la legalidad vigente porque nosotros pensamos que en algunos de sus puntos no ha sido así

no la ha reconstruido ni parece que tenga intención de hacerlo el gobierno vasco en nuestra opinión no ha cumplido con el artículo treinta y cinco punto dos de la ley

donde se dice que podrá exigir al propietario que no cuide del bien cultural que lo haga y en caso contrario realizar directamente las obras necesarias esta

también se ha incumplido la ley en su artículo treinta y seis pues se ha permitido el derribo de la cúpula del bellas artes sin previa declaración de ruina y sin cumplir la condición

por parte del gobierno vasco nos gustaría que nos aclarara si efectivamente usted considera que se ha incumplido la ley por parte del gobierno vasco si ha derribado la cúpula sin abrir el preceptivo expediente de declaración de ruina cuyo resultado podría ser o la desafectación o la negativa

por lo tanto lo que nosotros exigimos al gobierno es que asuma su responsabilidad y exigimos

inmediata de la cúpula por parte del propietario o la intervención subsidiaria de la administración y ahí en ese punto efectivamente el gobierno vasco tiene que asumir su

bien cultural de euskadi y es el primer responsable de la conservación del patrimonio cultural vasco el gobierno vasco por lo tanto tiene que ejercer sus competencias

responsable de cuidar de nuestro patrimonio por tanto lo que pedimos es que el gobierno vasco actúe de forma rápida y decidida para que san sebastián no acabe perdiendo este palacio es lo que le exigimos por lo tanto que actúe y que actúe ya que cumplan la ley la cúpula del palacio bellas artes de san sebastián de manera inminente y en todo caso

hay muchas personas que están interesadas en conocer su respuesta se compromete a restaurar este edificio y a reponer

sí o no qué es lo que piensa hacer esperamos su respuesta

disculpe mi sonrisa señor maneiro pero el intentar entender

de todas formas le voy a dar lectura al artículo treinta y cinco punto dos que usted ha dicho es decir cuando los propietarios son

la diputación foral correspondiente de oficio o a instancia del departamento competente en materia de cultura del gobierno vasco

y en caso contrario ordenar su ejecución subsidiaria por cuenta del propietario asimismo la diputación foral podrá realizar de modo directo las obras necesarias que resulten inaplazables para asegurar la integridad del bien la ejecución directa no obsta para que su costo deba ser abonado por el propietario si así resulta procedente

la obligación de conservación por parte del titular está estipulada por la ley de patrimonio y este gobierno hará cuanto esté en sus manos por asegurar su cumplimiento de hecho el gobierno vasco ha solicitado ya

en el plazo más corto posible al mandato legal establecido es decir que se reponga la cúpula del palacio bellas artes

y se repare el hormigón en las zonas afectadas por dichas filtraciones dando con ello cumplimiento al mandato legal establecido eskerrik asko uriarte andrea gai zerrendako

ginen jada mire el pasado treinta de junio tuvo lugar en lakua una reunión con ela en relación a esta cuestión

además responsables del departamento y del sindicato quedaron en que mantendrían el contacto en esa realidad la interlocución existe desde hace ya tiempo otra cosa es querer otorgarle una dimensión mediática al asunto

la empresa ha reconocido las irregularidades denunciadas por el sindicato y ha procedido a la subsanación de la misma ambas partes han constatado que con los precios con los que se están adjudicando las obras públicas es imposible el cumplimiento de los convenios colectivos aplicable a los trabajadores

el asunto se analizó y se comprobó que fueron los propios trabajadores naturales de asturias quienes pidieron trabajar durante dos festivos de euskadi

las empresas contratantes aseguran que se dan como mínimo las condiciones recogidas en el convenio del sector si no fuera así correspondería a la inspección de trabajo analizar el hecho

guardan una relación directa con las condiciones de las adjudicaciones públicas en este punto sí me gustaría explicarle cómo se llevan a cabo dichas adjudicaciones

eskerrik asko presidente andrea egun on denoi señores señorías hace ciento cincuenta y cinco años ya

que inició la profesionalización del colectivo de enfermería ya enviaba enfermeras a los domicilios a realizar consultas registraban la actividad publicaban notas hacían gráficos con los resultados y estudiaban

ciento cincuenta y cinco años después en qué situación está la enfermería y en que situación está la enfermería en euskadi

a fijarnos en tres aspectos prescripción enfermera recientemente se ha aprobado en madrid por el consejo de gobierno

de prescripción enfermera en el que retira prácticamente toda capacidad enfermera de hacer prescripción puesto que exige que cada vez que se vaya a hacer una prescripción

un tratamiento médico y una rehabilitación por tanto ha retirado toda posibilidad de desarrollo de la enfermería en lo que se refiere a la prescripción incluso retirando capacidades que ya venían realizando

consejero ha declarado que efectivamente va a recurrir este decreto en cuanto se se publique perdón y estamos de acuerdo con él creemos que es un gran retroceso para la profesión de enfermera de que se retire competencias desarrolladas y desarrolladas satisfactoriamente por la población y por el propio colectivo pero ya sabemos que los discursos son gratis qué pasa con la práctica de la enfermería en euskadi las enfermeras hoy tienen una gran capacidad una gran formación son tituladas tienen una gran también hacen especialidades y tienen voluntad y capacitación para desarrollar una tarea autónoma y qué ocurre vamos a mirar dos aspectos ya hemos visto que la prescripción enfermera en euskadi

qué pasa con la consulta de enfermería pues la consulta enfermera autónoma la que realiza la enfermera directamente con el paciente

se ha desarrollado prácticamente exclusivamente en la atención primaria y eso por supuesto empezó hace veinte años en euskadi y con gran oposición médica hasta el punto de que para ponerlas en práctica hubo que disfrazar los beneficios que

una consulta enfermera disfrazándolo de cara a los médicos para que pudieran permitir

que se desarrollara señalando que era para evitarles actividades burocráticas a los médicos es decir se hacían

continuidad de tratamientos de larga duración nada que pudiera ofender al médico en su desarrollo como profesión sanitaria lo mismo que ha ocurrido con

los primeros que se han que han declarado su gran conformidad con este decreto han sido los colegios de médicos concretamente en euskadi el colegio de gipuzkoa

decreto que retira la capacidad a la enfermería como digo en la consulta de atención primaria se está desarrollando se ha desarrollado pero de manera oscura difícil complicada y sobre todo no dañando a los médicos

y capacidad jerárquica y qué ocurre con la participación en la gestión pues aquí tenemos un nuevo real decreto que tampoco se ha publicado pero que pone en marcha las unidades de gestión clínica en euskadi se han puesto en marcha las unidades de gestión clínica en muchos hospitales y en algunas osi también por ejemplo en mendaro

de unidades de gestión clínica de momento se habían puesto en marcha cinco con la peculiaridad de que dos de ellas estaban dirigidas por enfermería

y la unidad de gestión clínica de hospitalización pero al parecer no gustaba a la clase médica y no gustaba por qué

económicos y también dijeron analizando las tareas realizadas de gestión que había determinadas

evitando autoconcertaciones decisión que tampoco gustó

y qué ha ocurrido yo voy a relatar lo que ha ocurrido ustedes interpretarán primero cesaron al gerente

que había propiciado este desarrollo esta capacidad de las enfermeras esta participación que por cierto se describe como obligatoria casi en la descripción de las unidades de gestión clínica la participación de todos los profesionales

como digo primero cese del gerente llega un nuevo gerente que

con unas decisiones o con unas propuestas en las que tenía que cesar inmediatamente la directora de enfermería

que diecinueve supervisoras de enfermería dimitieron dimitieron por un cese injusto y porque se sintieron todas censuradas en su desarrollo en su capacidad enfermera

la pregunta que subyace aquí es y ahora qué va a pasar aquí en euskadi qué va a hacer usted señor consejero porque mendaro

de desarrollo de la gestión clínica por su cuenta eran criterios aprobados en el departamento todo lo que se hizo en mendaro se hizo con acuerdo del departamento

y en este momento lo que queremos saber es sí el consejero se alinea exclusivamente en defender unos privilegios de la clase médica o entiende que por el bien del sistema sanitario en euskadi para que sea más sostenible y más eficiente hace falta la participación enfermera pero también con responsabilidades lo mismo que apoyamos

desarrolle una consulta autónoma en los hospitales también deseamos que participe en la gestión clínica y queremos saber cuál es su posición al respecto

me va a permitir que no siga el orden de los diferentes temas que ha mezclado en la interpelación a la hora de responderle porque muchos de ellos al menos yo no le veo ninguna relación entre sí la verdad es que he tenido que leer varias veces el texto de la interpelación para saber exactamente si quería que le respondiera a la prescripción de enfermería

al cese de la directora de enfermería de mendaro o si quería que le respondiera al modelo de gestión

que no es propio de mendaro es del conjunto de la organización bien

para destacar el papel de la profesión de enfermería en osakidetza y de la consideración que tanto desde el departamento de salud

tenemos ha planteado usted temas serios y que afectan a profesionales y pacientes como el llamado real decreto

luego también ha hablado como le he dicho del cese de un alto cargo en la administración pública vasca y del modelo de cuidados que como le he dicho al principio

son altos cargos del gobierno las direcciones de enfermería de las organizaciones de servicios

forman parte de los mismos la ley ocho barra noventa y siete de ordenación sanitaria de euskadi y el decreto doscientos cincuenta y cinco barra mil novecientos noventa y siete de estatutos sociales del ente público de osakidetza

los ceses y nombramientos de los altos cargos

estableciendo que es el gerente de cada organización sanitaria quien propone los nombramientos y ceses

quién tiene la potestad ejecutarlos es absolutamente normal

la dirección de un centro hospitalario o de una organización sanitaria integrada

y de su confianza en función del proyecto que en cada momento

y por lo tanto es también absolutamente habitual que plantee los cambios que considere oportunos hecho que la legislación permite y prevé

compareció ya ante la comisión de salud y consumo de este parlamento

por otro lado usted conoce en profundidad nuestro sistema sanitario y sabe que en los treinta y tres años de historia

ha sido excepcional pedir cuentas en el parlamento por el cese de altos cargos y al menos que yo recuerde

de un cese sustancie una comparecencia para dar su opinión sobre los motivos de la pérdida de confianza como ocurrió con la directora de enfermería

el empoderamiento de la enfermería en cuanto a la gestión cesando tanto a la directora de enfermería

de quirófano la directora de enfermería de la osi debabarrena efectivamente fue cesada llevaba quince años

parece tiempo suficiente para desarrollar el proyecto y asumir un recambio si así lo considera que en ese momento tiene la capacidad de decidir concretamente el gerente a lo largo de la presente legislatura han cesado por idéntico motivo ocho direcciones de enfermería

para nombrar a otras y en la pasada legislatura fueron cesadas

y no le veo nada extraordinario salvo que ninguno o ninguna de los anteriores ni en esta legislatura ni en la anterior

le tengo que corregir los términos ya que esta personas no fue cesada

y sencillamente la gerencia la aceptó como usted conoce tenía una relación muy próxima de parentesco

la mayoría nombradas por la directora cesada y que han preferido

susceptibles de ser o no confirmados por el gobierno sus organismos autónomos o los entes públicos cuando se considera oportuno en este caso concreto lo vuelvo a repetir

es una adecuación y actuación normal y que en ningún caso pone en entredicho la labor de la enfermería

y el gobierno vasco en su conjunto con el sistema sanitario y con todos sus profesionales también con el personal de enfermería en cualquier caso

me parece importante y me alegra que usted también se haya dado cuenta de la importancia de este grupo profesional en el sistema sanitario de euskadi

creo que es la primera vez que se interesa con preguntas o interpelaciones por el papel de la enfermería lo celebro este departamento de salud y este consejero

que la enfermería es una pieza clave de nuestro sistema sanitario me va a permitir recordarle las líneas generales del departamento de salud planteadas el dieciocho de febrero del dos mil trece

como la enfermería de práctica avanzada y alinearlas con las necesidades de cuidados que tienen los pacientes en el capítulo dedicado al empoderamiento de los pacientes y la autogestión dijimos textualmente

desde la enfermería sobre todo mediante acciones de educación sanitaria bien estructuradas para mejorar

y facilitar el control de los procesos crónicos y en el capítulo dedicado a la farmacia el dieciocho de febrero del dos mil trece dijimos consideramos la prestación farmacéutica como un elemento clave

del sistema sanitario por ello buscaremos la innovación en las formas de gestión de los servicios de farmacia y en la prestación vía

y receta de enfermería como ve desde el inicio ya hablábamos del importante papel de la enfermería el personal de enfermería es una parte esencial está presente en todos los ámbitos de actuación atención primaria urgencias hospitalización consultas unidades especiales transporte sanitario paciente activo educación para la salud consejo sanitario docencia e investigación y en la propia gestión del sistema

y relevante en los procesos esenciales un papel de cuidador esencial

integral del proceso de enfermería estamos apostando por el desarrollo de las competencias avanzadas

por un mayor protagonismo desde una atención sanitaria en un trabajo en equipo yo no creo

sin anestesistas y cirujanos no lo creo cualquier unidad de gestión clínica tiene que incorporar todos los profesionales estamos impulsando también las enfermeras gestoras como han hecho anteriormente estamos impulsando la formación con las nuevas especialidades de enfermería en relación al real decreto por el que se regula la indicación uso y autorización de dispensación de medicamentos de uso humano por parte de los enfermeros la denominada prescripción de enfermera

de cambiar la redacción original del real decreto una modificación que minusvalora al personal de enfermería y que además no respeta los acuerdos previos del consejo

no entendemos el cambio unilateral ni siquiera por cálculo electoral no entendemos que ni se nos haya comunicado ni explicado oficialmente como al menos hubiera sido de mínima cortesía aunque a decir verdad estamos acostumbrados después de los últimos cuatro años de despropósitos continuos en la política sanitaria del ministerio

sin conocimiento ni consenso de las partes y sin explicación alguna el pasado veintiséis de marzo del dos mil quince mostramos en el consejo interterritorial

nuestro apoyo al desarrollo de la prescripción de enfermería estamos convencidos que avanzar ordenadamente mejorar las competencias profesionales

gracias presidente andrea en algunas cosas coincidimos señor consejero

nada porque el relato de lo que ha ocurrido en mendaro usted se ha escapado en la normativa general no se puede esconder en eso oiga el relato de lo que ha pasado en mendaro

claro que sí aquí nadie duda de que los altos cargos y los cargos de confianza pues

no dudamos es que es el relato de lo que ha ocurrido usted lo quiere disfrazar como que llega un nuevo gerente y hace un nuevo equipo oiga usted conoce algún otro caso

luego cesan a la directora de de enfermería y luego diecinueve jefas supervisoras dimiten pues yo no conozco y por otro lado me extraña que le parezca mal que traigamos estos temas aquí

mejor funcionamiento para osakidetza y ese es el deseo que nos mueve

que si todo está bien hecho usted sea capaz de explicárnoslo no nos venga a decir que es solo porque existe el derecho a hacerlo el derecho a hacerlo sí que existe

por qué el nuevo no es capaz de explicar más que no tengo confianza en la nueva directora de enfermería pero si no ha podido tener tiempo ni de confianza ni de desconfianza

de mendaro ya sabíamos quienes iban a ser nombradas antes de que lo fueran por la dirección porque ya un jefe médico lo había comunicado por el hospital eso le parece a usted también normal igual es que es también transparencia

dirección médica criterios médicos en contra del desarrollo de la profesión autónoma de la enfermera hay en todas las decisiones de mendaro en todas lo que hay es un pulso un enfrentamiento entre la dirección médica

contra las enfermeras y el gerente su obligación es resolver un conflicto con respeto y dignidad a todas las partes y aquí

ni con respeto ni con dignidad ni desde luego por la aportación que habían hecho durante como usted dice tanto tiempo al hospital de mendaro nada más y muchas gracias

señora roncal mire está usted intentando hacer una porrusalda

los ingredientes parecen malos primero el

que no fue cesado no tiene nada que ver con el proyecto de enfermería señora roncal los cambios en las direcciones se hacen cada vez que llega un gerente siempre es así siempre es así ha sido así en esta legislatura

debería saberlo no se cambia al de tres años salvo que haya un problema se cambia cuando uno llega le parece a usted poco quince años en el ejercicio del gobierno sí por qué es el único

el recambio de una dirección de enfermería por qué es la única que le preocupa y no le preocupan las anteriores no le voy a recordar a usted episodios gloriosos de recambios en otros momentos voy a insistir mire voy a insistir

el proyecto de enfermería de mendaro es exactamente igual que el del resto de proyectos del resto de organizaciones sanitarias integradas de gipuzkoa

el proyecto de gestión clínica nosotros estamos en contra

de que se legisle de forma básica en lo que entendemos que es una herramienta de gestión

deben tener un margen de flexibilidad y no debe ser legislación básica del estado segundo no comprendemos que la gestión clínica que es la incorporación del conjunto de los profesionales que se encargan de un servicio

exclusivamente en una categoría profesional sea esta la que fuere no es un problema de médicos y de enfermeras yo no entendería

donde no hubiera enfermeras auxiliares y celadores de la misma forma que me parece un disparate hacer una unidad de gestión clínica en un quirófano

ni los cirujanos lo podemos llamar otra cosa para tener servicios por categorías

se llaman las unidades de enfermería se llaman los servicios médicos se llaman el área administrativa de celadores eso ya ha habido siempre por lo tanto

pues no deja de ser más que el servicio de enfermería de quirófano

ni nada lo que ha habido es una orientación nueva del centro en función de lo que interpreta de lo que tiene que ser un gerente de máxima experiencia

en algunas categorías necesitaba un recambio no hay nada más señoría ahora igual es que pasa usted más tiempo en mendaro que yo pero bueno si es así

de que me lo explique y me lo cuente eskerrik asko eskerrik asko sailburu jauna gai zerrendako hogeita hirugarren puntua galdera cristina ruiz bujedo

eguerdi on mejor gracias señora presidente señora

tres meses que el gobierno vasco volvería a poner en marcha el ascensor de begoña

ha funcionado en bilbao durante sesenta y cinco años desde mil novecientos cuarenta y nueve y dejó de hacerlo hace un año y cuatro meses me atrevería a decir que llega a la categoría del funicular de artxanda o de la grúa carola casi

hasta este momento pero este ascensor aparte del servicio que

sabe de hecho se trata de un edificio protegido por el gobierno vasco pertenece al racionalismo expresionista y por eso no se trata solo de arreglar

más sencillo sino que hay que rehabilitar toda la infraestructura entendemos que el proceso de reversión y acondicionamiento

se hiciera este anuncio de intenciones por parte de su departamento no sé si está usted ya en condiciones de ser más concreta de dar fechas de confirmar si finalmente los bilbaínos van a poder contar de nuevo con el

cuándo van a contar de nuevo los bilbaínos con el servicio del ascensor de begoña gracias

sí señora ruiz efectivamente ha habido una serie de complicaciones diría yo en la tramitación administrativa de la reversión y de los diferentes trámites que hay que hacer

en ese bien y poder llevar a cabo las actuaciones que necesitamos

que son la solicitud de entrada en las instalaciones formulada ante el juez

y todo ello también sin perjuicio de la resolución que adopte la tesorería general de la seguridad social en relación con la adjudicación que ha hecho por subasta de la finca donde se encuentra la lonja de entrada a los citados ascensores de begoña

de los bienes a la administración a nuestra administración no podemos determinar con precisión ni el estado de conservación de los citados bienes ni la fecha de puesta en marcha

los trámites administrativos estuvieran en esa situación lo cual

cómo nos encontramos pero en cualquier caso entiendo que en cuanto se resuelvan que no sé qué tiempo puede llevar

para definir cuáles son las reparaciones que a eso se ha comprometido incluido el coste y los plazos de ejecución y así formulado lo que hemos interpretado todos es que hay una firme voluntad de intención de hacerse cargo de esa infraestructura otro tema vendrá después de quién gestione la misma si lo hará el gobierno vasco

pero al margen de que no pueda contestar a mí pregunta porque no puede concretar plazos puesto que los trámites administrativos

cómo hay que intervenir y qué obras hay que hacer difícilmente se pude cuantificar en tiempo y en recursos

más tranquila y más satisfecha si de su respuesta yo dedujera inequívocamente que al margen de lo que diga el estudio

y se va a poner en servicio bien por el gobierno vasco bien por el ayuntamiento de bilbao

de los problemas el tres de septiembre compareció el adjudicatario

y manifestó su oposición a la entrega de los bienes en el acto de recepción y también puso un recurso contencioso administrativo que en este momento se tramita por el tribunal superior de justicia del país vasco por eso nos resulta muy complicado dar fechas porque no

además también hubo un anuncio de subasta de la lonja que está afecta al servicio público desde el gobierno se advirtió a la tesorería general de la seguridad social teníamos esa afección pero sin embargo se siguió adelante con la adjudicación y resultó adjudicataria inmobiliarias bilgomu dos mil doce nos hemos puesto en contacto con ellos también con el adjudicatario advirtiéndoles que han sido adjudicatarios de un bien afecto a un servicio público

desde el dieciséis de julio de dos mil quince en cuanto a la reanudación del servicio

el otorgamiento de autorización para la entrada a las instalaciones destinadas a la prestación del servicio público por parte de la concesionaria ascensores a begoña por las siguientes razones abandono de la concesión declaración de caducidad requerimiento del ayuntamiento de bilbao instando mantener el área de seguridad de las instalaciones intención del gobierno vasco de reanudar el servicio

y el juzgado no nos ha dado ninguna contestación hasta el momento también el veintidós de septiembre del dos mil quince la directora de patrimonio y contratación solicitó al registro de la propiedad número siete de bilbao que proceda a la notación preventiva de la afección de las fincas de la lonja y de la huerta al servicio público de ascensores de begoña y el derecho

a favor de la administración de la comunidad autónoma de euskadi como consecuencia de la caducidad de la concesión y tampoco por parte del registro de la propiedad hemos recibido hasta el momento ninguna contestación estamos a la espera de que ser resuelvan todos estos trámites y hablando con unos y otros interlocutores para

poder entrar en las instalaciones para determinar el estado de conservación las obras necesarias y la posibilidad de la ejecución de esas obras a futuro